buenas tardes a todos tal como recuerda el informe de octubre de dos mil trece emitido por el comité de seguimiento y asesoría para la capital europea de la cultura

de la unión europea que pretende destacar la riqueza y la diversidad de las culturas europeas y las características que comparten así como promocionar

de europa de acuerdo con el artículo diez de la decisión que rige efectivamente esta cuestión la labor del comité consiste en monitorizar la implementación de los objetivos y los criterios de acción y ofrecer apoyo y consejos a las capitales europeas de la cultura

el comité de seguimiento de la capital plantea ciertamente como todos ustedes saben severas críticas que esta iniciativa esta iniciativa de upyd pretende

que se superen a los responsables el comité señala que el programa artístico y el plan de comunicación de la capitalidad europea de la cultura deben asegurar

europea y la ciudad y los ciudadanos sean abordados apropiadamente para evitar todo tipo de tropismo que resultara en la organización de una celebración de la cultura vasca dirigida exclusivamente al público local la dimensión

para reforzar y popularizar la dimensión europea que ya estaba presente en el dossier de la candidatura el comité recomienda en todo lo posible al programa artístico presentado en la fase de solicitud y añade que el foco del programa cultural debería ponerse en crear conciencia en europa sobre la riqueza y diversidad de las culturas y las lenguas minoritarias que existen en los distintos países europeos

que confíe en lo más posible en las personas de su equipo que han tomado parte en el proceso desde la fase de candidatura y urge a donostia dos mil dieciséis a que para febrero para febrero de dos mil quince tenga un programa artístico cerrado

españoles y europeos el comité percibe y avisa de ello que se han destinado demasiados recursos a comunicación salarios

en detrimento del programa artístico e invita a donostia dos mil dieciséis a reconsiderar este reparto bruselas pedía en este amplio informe

europea y advertía por tanto del riesgo de localismo a partir de la lectura de este dictamen a partir de la lectura de este informe nosotros planteamos esta propuesta para exigir a los responsables de donostia

a cumplir todas y cada una de las recomendaciones realizadas por el comité de seguimiento y asesoría tengan especialmente en cuenta las que se refieren a la dimensión europea y al riesgo de localismo y además de esta propuesta de este primer punto lo que pretendíamos hacer en esta proposición no de ley es instar

a cumplir con sus compromisos de financiación por lo tanto dos objetivos fundamentales cumplimiento de las recomendaciones realizadas por el comité de seguimiento

de los compromisos de financiación a partir de ahí los diferentes grupos han presentado distintas enmiendas por lo que se refiere a la enmienda del grupo popular

la correspondiente transaccional por lo que se refiere a la enmienda de eh bildu

a pedir dinero pero omite tener en cuenta el informe emitido por el comité salvo para pedir dinero

insta a los responsables de donostia dos mil dieciséis a constituir una comisión asesora u órgano consultivo al amparo de la fundación

para que puedan participar activamente y aportar su conocimiento experiencia y redes de trabajo en los proyectos estratégicos de san sebastián dos mil dieciséis

forma parte de las recomendaciones realizadas por el comité y por lo que se refiere al grupo nacionalistas vascos ha pasado de proponer a través de su enmienda instar a los responsables a cumplir

a poner como condición para firmar nuestra transaccional que no se incluya precisamente eso que ellos proponían ahora proponen que se señale a seguir cumpliendo las recomendaciones realizadas por el comité en nuestra opinión no tiene ningún sentido porque estas recomendaciones no se están cumpliendo

de la iniciativa es por lo tanto ciertamente curiosa la enmienda del partido nacionalista vasco sobre todo su cambio

cuando se presentó esta iniciativa en fin recogiendo por lo tanto lo fundamental de la cuestión hemos

socialista que recoge ya digo lo fundamental y que creo que cualquier partido político que quiera

debería firmar sin embargo pues es evidente que el partido nacionalista vasco está a otras cuestiones y tiene su propia estrategia en todo lo que se refiere a san sebastián

en concreto a los hechos me remito no solamente en lo que se refiere a esta cuestión sino por ejemplo en lo que se refiere

a la directora del proyecto evidentemente ya digo que hemos tenido la sensación que el partido nacionalista vasco

nada con el resto de grupos nada con upyd y que desde un principio su idea era avalar las tesis de eh bildu en fin

el documento el informe lo conocen todos ustedes perfectamente

severas críticas no voy a hacer una lectura pormenorizada del mismo pero son muchas las críticas que se plantean y lo que nosotros queremos es que el proyecto cumpla

creo que es algo que los ciudadanos esperan los ciudadanos donostiarras los ciudadanos guipuzcoanos y los ciudadanos vascos queremos que el proyecto salga bien que sea un éxito que no dejemos pasar esta oportunidad que no hagamos el ridículo en europa que este proyecto no se convierta

a europa que sea un proyecto abierto cultural esto es por lo tanto lo que nosotros planteamos ya digo que el partido nacionalista vasco ha firmado una transaccional con eh bildu creo que esto se debe a que existe una especie de pacto soterrado

no sé si exactamente un pacto soterrado pero en todo caso una especie de pacto de hierro en todo lo que se refiere a donostia dos mil dieciséis ya digo bien sea para tapar fraudes

las recomendaciones del comité ya sea para aprobarles los presupuestos en el ayuntamiento de san sebastián y otras cuestiones semejantes por lo tanto nuestro deseo nuestro propósito

para que este proyecto tenga dimensión europea que donostia dos mil dieciséis no pueda ser utilizada por bildu para vender su historia que no dejemos pasar esta oportunidad que no convierta bildu la capitalidad

y desde luego que no conviertan tampoco eh bildu y pnv

sería ya digo una oportunidad perdida que se hagan los trabajos pendientes

que se aproveche esta oportunidad histórica que se respete el proyecto original que se corrija la falta de dimensión europea que se corrija

que se ha planteado hasta ahora que se corrija la falta de liderazgo y los retrasos habidos en fin que se cumplan todas y cada una de las recomendaciones planteadas por el comité no son ni siquiera unas recomendaciones planteadas inicialmente por upyd

por la propia comisión por el propio comité y nosotros hemos querido traer este asunto por lo tanto y por ello a este parlamento nada más y gracias eskerrik asko

buenas tardes y brevemente porque el señor maneiro ha hecho un repaso y una reflexión interesante sobre el informe del comité de

capitalidad europea de la cultura que es claro y que ahí está y que se redactó a finales de octubre y que todos conocemos la iniciativa

es una importante manifestación de la unión europea que pretende

la riqueza y la diversidad de las culturas europeas y las características que esas culturas europeas comparten así como promocionar un mayor conocimiento un mayor entendimiento mutuos entre los ciudadanos de europa esa decisión

una decisión del consejo de ministros de la unión europea de dos mil seis y según esa decisión polonia y españa son los dos estados miembros designados para acoger la manifestación capital europea de la cultura

y sobre esas decisiones europeas

precisamente de que españa tenga un feliz desarrollo de la capitalidad cultural europea en san sebastián dos mil dieciséis como tuvo

el precedente esta ahí una feliz andadura en la capitalidad

seguir exigiendo que los pasos que den los órganos y los consejos de la organización de la capitalidad cultural en san sebastián

efectivamente sobre bases sólidas sobre verdaderas bases artísticas sobre auténticas bases culturales sobre verdaderas bases europeas

como no puede ser de otra manera siguiendo las recomendaciones que el comité de seguimiento y asesoría por la capitalidad europea de la cultura ha hecho y que todos conocemos y que la verdad son de sentido común

el portavoz precedente el proyecto de la capitalidad europea de la cultura se debiera de estar desarrollando ya sobre pasos mucho más visibles y mucho más reconocibles es o mejor dicho debiera ser una capitalidad dinámica que sí empezó el día que se aprobó la decisión mil seiscientos veintidós barra dos mil seis del consejo de ministros de la unión europea pero que tendrá su culmen

ya se debiera de tener debiera de haber una expresión clara una expresión efectiva de esa capitalidad y eso aún no existe eso

se consiga hay que recordar y pensar reflexionar sobre dos cuestiones por qué fue seleccionada

y dónde estamos esas son las cuestiones importantes de cara a que ese dos mil dieciséis alcance el éxito que todos pretendemos

y que desde luego hay que excitar de alguna manera como esto hoy no lo sabemos bien lo que está pasando

no conocemos bien lo que pasa ahí dentro febrero es un mes importante

de este parlamento va a ayudar puede ayudar a seguir por el camino correcto es decir entender

la capitalidad a españa la capitalidad a san sebastián en este caso en relación con la organización de la capitalidad europea de la cultura y desde luego como ya se ha manifestado y es el objeto de esta

del comité es decir un proyecto europeo con mayúsculas que huya de reduccionismos que huya de simplificaciones

a europa y al mundo desde san sebastián desde donostia vuelvo a decir como he dicho antes febrero es un mes importante y por eso muy procedente en este mes la presente iniciativa

planteó una interpelación al gobierno pensamos que el gobierno vasco está comprometido pero de todas maneras vemos no por parte del gobierno pero sí

que también pretendemos debatir en una moción que sobre cuestiones distintas a la que plantea esta iniciativa pues queremos apuntalar en una próxima moción que este pleno yo creo que eso es importante y por eso es bueno que este parlamento se preocupe porque

europea de la cultura que se producirá

hemos firmado una enmienda transaccional de referencia e importante donde

a cumplir las recomendaciones realizadas por el comité de seguimiento y asesoría capitalidad europea de la cultura quién mejor para hacer las propuestas

por eso mismo es de cajón es de sentido común se insta a los responsables de donostia san sebastián dos mil dieciséis a constituir una comisión asesora órgano consultiva al amparo de la fundación eso

de seguimiento y asesoramiento de la capitalidad europea de la cultura e insta a todas las instituciones implicadas a cumplir con sus compromisos de financiación eso es una cuestión que también tiene que garantizar con normalidad el éxito

no tiene que haber simplificaciones no tiene que haber reduccionismos tiene que haber

y desde san sebastián qué mejor sitio esperemos que algunos no lo utilicen como ya estamos sospechando para otras cuestiones está bien claro que

es nuestra obligación desde el parlamento vasco procurar que el éxito se garantice vigilar la andadura no tratar de imponer nada ni de tener injerencias ni de inmiscuirse pero sí que tratar de garantizar que todo eso sea un éxito para san sebastián

gipuzkoa para el país vasco para españa y para europa muchas gracias eskerrik asko barrio jauna eh bildu taldearen ordezkaria den

bertakoan lelopean y así es una oportunidad histórica maneiro jauna

bat cumplir las recomendaciones realizadas se están cumpliendo el parlamento vasco

se está constituyendo hirugarrena al cumplir con sus compromisos de financiación

señorías vamos a ver señora breñas no es verdad lo que usted acaba de decir

la comisión asesora no es verdad y se lo digo porque ayer el alcalde de san sebastián en la comisión municipal dos mil dieciséis que tuvo lugar en el ayuntamiento de san sebastián no lo expresó así así que alguien está equivocado y desde luego de actualizado nada yo pretendo en mi intervención en la medida de lo posible no reiterar lo que algunos otros portavoces ya han señalado con anterioridad

porque estando de acuerdo con ella además consideramos absolutamente imprescindible instar a los responsables de donostia san sebastián capital europea de la cultura dos mil dieciséis a constituir una comisión asesora u órgano consultivo al amparo de la fundación

artistas además de empresarios etcétera para qué

experiencia y redes de trabajo en los proyectos estratégicos de san sebastián dos mil dieciséis nuestra enmienda constituye una recomendación del propio comité a la que el alcalde de san sebastián

imprescindible por tres motivos primero porque va a asegurar una visión diversa y plural de la cultura en segundo lugar

que deje atrás los localismos que ha echado en cara el propio comité y en tercer lugar porque los socialistas vascos estamos convencidos que gran parte del éxito en la obtención de la candidatura

en este proyecto durante tres años desde septiembre de dos mil ocho y digo esto porque en septiembre de ese año de dos mil ocho se celebraron en el teatro victoria eugenia los primeros encuentros abiertos a toda la ciudadanía

diversos agentes sociales destacados especialistas de la cultura del deporte de la filosofía de las artes escénicas de la gestión cultural de la universidad y de la empresa

y retos de emprender un proceso de candidatura e identificar los posibles enfoques del proyecto más tarde mirando hacia fuera se buscó un contraste europeo

explicaron de primera mano su proyecto para ser capital europea de la cultura en dos mil nueve se organizaron multitud de reuniones para analizar las necesidades problemas y cuestiones que se debían afrontar en el proyecto y recoger además propuestas para la definición de las ideas fuerza y de los ejes del programa cultural de la capitalidad europea de la cultura

centros de enseñanzas universidades comercio hostelería teatro

artistas galeristas empresas de gestión cultural jóvenes estudiantes ciudadanía polaca incluso que vivía en san sebastían personas con diversidad funcional inmigrantes personas mayores además de las propias personas

donostia san sebastían dos mil dieciséis para informarse del proyecto y contribuir con sus propuestas participaron todos los barrios de la ciudad para contrastar e incluir la dimensión territorial más micro desde la fase inicial además de una jornada específica para analizar

y del análisis de las reflexiones de aquellas aportaciones e ideas recogidas resultó

que ordenaba y estructuraba toda la información y además se configuró un grupo operativo de treinta personas un grupo plural y diverso compuesto por profesionales y por ciudadanía que a partir de aquel mapa elaboró una propuesta de ideas fuerza y de ejes temáticos que se trasladaron a la comisión

en el que entidades colectivos instituciones empresas profesionales y creativos aportaron sus opiniones y propuestas de programación todo esto

este relato pues para que sean todos ustedes conscientes un poco más de la gravedad de lo que está ocurriendo y para mostrarles la profunda preocupación que existe

que durante tres años se llevó a cabo y que el jurado de la propia candidatura tuvo en cuenta a la hora de resolver la misma mediante un informe de valoración por el que elogió san sebastían por la muy alta calidad de su programa destacando además la original presentación del proyecto y el reflejo del entusiasmo

y hoy hoy aquella ciudadanía implicada y entusiasta ha perdido esa ilusión no sabe nada del proyecto no hay un plan de comunicación y la energía ciudadana aquella energía ciudadana que impulsó la candidatura esa no sabemos dónde está

que iba desde el año dos mil doce hasta el dos mil veinte y que estaban planificadas en colaboración con los agentes locales

la fundación donostia san sebastían dos mil dieciséis es una nueva estructura jurídica que gestiona el proyecto de acuerdo con la orientación conceptual y con la misión y principios orientadores del proyecto seleccionada que eran

participación y transformación social y si no se hacen realidad las recomendaciones del comité de seguimiento y de asesoría no solo la financiación

están en cuestión sino que además se habrá frustrado el gran proyecto estratégico

para un momento en el que se pretende iniciar la salida de una crisis una oportunidad que difícilmente vamos a poder tener donostiarras guipuzcoanos guipuzcoanas

llevamos dos años y nueve meses perdidos y a pesar de contar con un nuevo equipo técnico

no se sabe qué avances se han producido se desconocen los proyectos que se van a abordar falta un plan de comunicación en la ciudad como les decía

el alcalde no cuenta no dice qué es lo que está haciendo y por qué está trabajando en el gobierno vasco la consejera de educación política lingüística y cultura nos dijo el pasado viernes

se desconoce si hay algún plan para conseguir espónsores patrocinios nada se sabe de la financiación privada que estrategia se va a tratar o a trazar

empleo entre los jóvenes emprendedores y artistas vascos no hay ningún plan turístico

plazas hoteleras y quedan menos de dos años y

hemos perdido casi tres años en el ponte bien y estate quieto con los cambios de equipos directivos y técnicos

ni dos años para que llegue ese uno de enero del dos mil dieciséis pero aquí nadie tira del carro aquí no se avanza aquí todo se va dejando para el más adelanta no sé si esperando la intersección de algún santo como dijo un ministro no hace mucho algún milagro o alguna inspiración y

de que un proyecto estratégico para euskadi como este no se improvisa de la noche a la mañana que hay que estar encima de él día y que hay que contrastarlo que hay que trabajarlo con ganas

altura de miras y ni yo ni los socialistas vascos al día de hoy señorías estamos percibiendo que ese trabajo que ese empeño por sacar adelante

llevando acabo por eso no compartimos los términos de seguir haciendo o seguir trabajando que bildu y el partido nacionalista vasco empleaban en su enmienda hay que trabajar hay que constituir la comisión

y esto o se lo creen o no saldrá adelante y los responsables

es una de las doce provincias que conforman el reino de los países bajos

legebiltzarkideok lehendakari sailburua como decía frisia es una de las doce provincias que conforman el reino de los países bajos al igual que las demás provincias está gobernada por un comisionado o comisario designado por el monarca y una cámara legislativa elegida mediante sufragio universal

frisia se distingue de las otras once provincias porque tienen su propio idioma

la lengua de frisia tiene además sus propias distinciones o subdialectos con otros grupos dialectales pertenecientes a la familia lingüística

y que se encuentran presentes también en las partes septentrionales de alemania ya que frisia perteneció en el siglo diecisiete

cuando se separó para unirse a los países bajos con total normalidad

económicamente frisia es principalmente una provincia agrícola de aquí procede el célebre ganado frisón

el turismo es un renglón importante sobre todo en la región de los lagos

en cuanto al deporte uno de los principales atractivos de la provincia es el patinaje sobre hielo que atrae deportistas y aficionados de todo el país cuando las condiciones climáticas lo permiten en invierno cuando los canales y lagos están suficientemente congelados

tradicional vuelta de las once ciudades un circuito de patinaje sobre hielo de doscientos kilómetros la capital de frisia y esto es lo importante es

ari direla lanean esan zuen en palabras de uriarte el comité europeo

que no olvidaran que la iniciativa de capital europea de la cultura no es un acontecimiento político sino cultural un aspecto crucial a tenor de la consejera de cultura si queremos garantizar el éxito del proyecto la consejera recalcó además que este gobierno acata

como hizo saber entonces el programa cultural deberá ser presentado al patronato para finales de este mes o marzo y una vez aprobado por el mismo será presentado en junio ante bruselas será entonces cuando las instituciones puedan emitir un juicio claro y concreto sobre el nivel de cumplimiento de los objetivos marcados como dijo la señora

sí gracias presidenta sí señora mendizabal muy divertida su intervención y muy evidente una cosa que ha dicho eso de que la consejera de educación acata las recomendaciones del comité

no se las cree pero en fin no le queda otra que decir que las acata y que

cumplirlas aunque según usted y esto no se lo cree nadie ya se están cumpliendo no no se están cumpliendo las recomendaciones ustedes y ustedes niegan

está ahí hay una serie de problemas que tienen que resolverse hay una serie de disfunciones que tienen que corregirse y de momento no se ha hecho absolutamente

no se ha hecho absolutamente nada sigue habiendo retrasos sigue habiendo falta de liderazgo esta es la realidad y lo que percibimos los ciudadanos donostiarras principalmente

de los vascos que el proyecto va mal este es el asunto que el proyecto va mal y que no se está respetando el gran trabajo inicial que se hizo en su momento y no se está respetando el proyecto original y que se pretende convertirlo en otra cosa ustedes tienen que tomarse el asunto en serio y tienen que comprender qué es de lo que estamos hablando cuando hablamos de defender la cultura la cultura global efectivamente de lo local a lo global

abierta alejada de localismos alejada de ombliguismos y trabajar trabajar a fondo el proyecto injerencias políticas no pero compromiso sí

mucha preocupación por lo que se está haciendo o mejor dicho por lo que no se está haciendo hay algunos representantes políticos que van caminando a paso de caracol porque además no entienden de estas cosas y no creen en este tipo de cuestiones y por eso es fundamental esta propuesta y que este parlamento exija que se cumplan las recomendaciones emitidas por el comité y que

cumplan los compromisos de financiación que se respete el proyecto original que no se desvirtúe que no se pretenda convertirlo en una cosa distinta

que no se tire el trabajo realizado durante largos años por la borda esto es lo que estamos pidiendo se hizo un buen trabajo durante un tiempo que esto no se tire por la borda esto es lo que tienen que hacer los responsables tomarse este asunto en serio porque importa e importa mucho al conjunto de los ciudadanos que sea

europeo que abandone localismos y ombliguismos ya comprendo yo que los nacionalistas no entienden demasiado de estas cosas pero nuestra obligación es recordárselo permanentemente no vamos a mirar para otro lado vamos a estar vigilantes para que el proyecto tenga éxito y no el ridículo en europa esto es lo que pretendemos con esta iniciativa no inventamos ningún tipo de problema no nos hemos inventado problemas están ahí perfectamente escritos en ese dictamen están ahí y ustedes han tenido la posibilidad están aquí en estas páginas perfectamente descritos cuáles son losprogramas cómo vamos a firmar nosotros una transaccional que inste a los responsables de san sebastián dos mil dieciséis a seguir cumpliendo las recomendaciones realizadas si estas recomendaciones no se están cumpliendo en absoluto lo dice el dictamen hombre

avance habrá habido en alguna pequeña cuestión evidentemente pero en lo fundamental no se ha corregido dimensión europea localismo liderazgo etcétera todo esto

ustedes niegan los problemas algunos de ustedes no los niegan el propio representante del partido nacionalista vasco en el ayuntamiento de san sebastián mejor escuchar las recomendaciones ahora cuando hay tiempo de aplicarlas pues eso es lo que efectivamente nosotros pedimos por lo tanto injerencias políticas

mucha preocupación y más preocupación después de la transaccional que ustedes han firmado y después de los discursos que algunos de ustedes han planteado en esta

al partido popular y al partido socialista no solamente la firma de la transaccional sino sobre todo los argumentos que han expuesto también

muchas gracias señora presidenta mire señora breñas lo que dice el comité de seguimiento y asesoría de las capitalidad cultural europea por respeto a la distribución del presupuesto el comité percibe que se han destinado demasiados recursos

a considerar este reparto eso es un motivo de preocupación y de eso podemos hablar se ha identificado un fallo en ese sentido queremos llamar la atención sobre esa cuestión entre otras cosas que ya se han recordado antes no se tiene que enfadar señora breñas porque

distorsiona los debates los subjetiviza

en este momento es que busquemos la corrección seguir un proyecto que estaba designado ese proyecto y trasladar y caminar por ahí

lo que tiene que ser lo que debiera de ser que a veces no es

yo creo que no tiene que enfadar ustedes con nosotros

usted ha hecho alguna serie de preguntas y yo creo que le tengo que contestar que comprenda que haga una reflexión sobre lo que es de una vez usted y sus representantes en san sebastián

el riesgo de manipular no que comprendan de verdad que hagan esa reflexión de verdad

usted ha dicho en un momento de su intervención que nos da igual san sebastián dos mil dieciséis usted ha dicho eso señora breñas que a nosotros que nos da igual

porque es la imagen de españa es la imagen que en dos mil dieciséis españa va a dar a europa

nos preocupa y mucho y por eso estamos hablando de esa cuestión a ver cómo ustedes administran esa cuestión relevante de la imagen

mucho no nos da igual señora breñas así que ese argumento por favor no lo vuelva a utilizar porque no es verdad señora mendizabal yo sí creo que la consejera no solo acata sino también yo creo que también

también están preocupado por esta cuestión yo lo intuí de alguna manera

de seguir abordando ese tema yo creo que sí que es verdad que alguna

competencia para controlar la acción del ejecutivo y del gobierno y que en ese sentido está perfectamente implicado en ese importante proyecto que estratégico de país que es la capitalidad cultural europea dos mil dieciséis pues nosotros nos interesemos

en relación con su enmienda inicial de exigir el cumplimiento a que se siga cumpliendo usted se dio cuenta al principio que no se cumplía

de acercarse a eh bildu y tener esa intente en relación con estas cuestiones sobre las cuestiones que afectan a san sebastián

pero nos quedamos desde luego con su enmienda inicial y desde luego que es el espíritu que el señor

traemos a este debate desde lo constructivo la verdad es que ha sido muy emocionante la información sobre frisia ojalá sea capital europea después de oír

descripción sobre las vacas frisonas y esas cuestiones ojalá sea porque es cierto que eso es europa también y desde de esa parte de bélgica perdón desde esa parte de holanda y desde esa parte de europa

será bueno que europa se siga enriqueciendo o sea que en ese sentido pues estupendamente señora mendizabal acontecimiento político

lo dijimos también el otro día acontecimiento cultural por eso es lo importante que algunos sí que quieren politizar

y desde luego nosotros lo que pretendemos es que desde euskadi se dé ese lado artístico ese lado cultural de verdad

es tan desalentador algunas de las cuestiones que se leen en relación

de capitalidad cultural leíamos recientemente en una entrevista a la directora cultural de donostia dos mil dieciséis

le oíamos estarán presentes los nombres de referencia del arte vasco y decía no estarán presentes chillida y oteiza chillida es el más grande de los artistas vascos

y seguramente el más grande de los artistas europeos muchas gracias eskerrik asko barrio jauna eh bildu taldearen ordezkaria den breñas andrea

sí gracias presidenta señora breñas

que nos va a llegar el dos mil dieciséis y aquí nadie ha movido nada nadie ha hecho nada

europea los socialistas vascos decíamos que este proyecto estratégico requería de tres premisas para su éxito liderazgo apoyo y socialización del proyecto

se buscó la cohesión de las fuerzas políticas a nivel local territorial y de país se trabajó y se consiguió el apoyo interinstitucional

y de participación ciudadana que construyó un proyecto el de hacer de la cultura un instrumento

entre las personas por encima de cualquier diferencia social religiosa ideológica económica identitaria o lingüística la sociedad donostiarra guipuzcoana y vasca creyó en aquel proyecto y se implicó a tope para sacarlo adelante

crisis de liderazgo porque nadie asume ningún liderazgo porque nadie tira del carro lo único que hay es el ya voy a hacer que dice el alcalde que

tras interpelación deja pasar el tiempo sin tomar decisiones

lo que está provocando de verdad se lo digo desilusión y sobre todo desinterés de la ciudadanía que es lo más grave

por el que tanto se luchó cuál es el alcance y la dimensión de esa capitalidad y cómo puede sentirse aquella ciudadanía que trabajó tanto cómo puede sentirse hoy involucrada e implicada el apoyo económico interinstitucional también está en crisis con dudas y más dudas sobre la planificación artística y cultural que se va a llevar a cabo y por tanto también con dudas institucionales sobre el dinero a poner y cuándo

proyecto que sabemos que haberlo lo hubo porque lo conocieron las miles de personas que participaron en su elaboración y con el que se comprometieron pero que a día de hoy no sabemos en qué se va a concretar

nada absolutamente nada la consejera nos dijo

en la reunión de la fundación el alcalde ayer tampoco dio cuenta de cómo iban las cosas en la comisión municipal dos mil dieciséis demasiadas dudas e incertidumbres que no acaban de despejarse

poco tiempo para implementar un proyecto que no acaba en el dos mil dieciséis sino que se prolonga hasta el dos mil veinte

llevamos tres años perdidos y señora breñas usted tiene paciencia es que son tres años perdidos

hay un nuevo equipo técnico quedan menos de dos años para desarrollar la capitalidad cultural y es imprescindible que alguien lidere el proyecto que alguien se moje que alguien se involucre

que habla el comité de seguimiento asesoría pero es que alguien cree normal que después de que ese informe dice cómo es posible que la web de relaciones públicas de la capitalidad europea dos mil dieciséis

ni en francés que la tiene en euskera y en castellano me quieren decir ustedes

normal en una capitalidad europea para el dos mil dieciséis y usted señor breñas en su primera intervención me dice como gran logro de la fundación o del equipo técnico mejor dicho

un logro si vamos a este ritmo el dos mil veinte se nos va a quedar todavía demasiado próximo

porque me impliqué mucho en esta historia y duele que nadie sepa cómo va evolucionar

este es un gran proyecto una gran oportunidad un desafío que esperamos de verdad que encuentre el rumbo adecuado para llegar a buen puerto porque si no no nos lo van a perdonar ni la sociedad donostiarra ni la sociedad guipuzcoana ni la sociedad vasca esto no se perdona dejar pasar un tren así

a salir de una crisis que ha hecho mucha mella en las ciudades mucha mella en cualquier ciudad española pero especialmente en ciudades vascas

eskerrik asko berriro ere bueno el informe del comité europeo es de octubre pasado y estamos a mediados de febrero

y no me van a negar nada de eso voy a leer unos trozos

en la página doce dice el comité insiste en que el programa artístico del plan de comunicación de la capital europea de la cultura deben asegurarque los criterios de la dimensión europea y la ciudad y los ciudadanos

que resultaran en la organización de una celebración de la cultura vasca dirigida exclusivamente al público local tropismo

movimiento de orientación de un organismo sésil como respuesta a un estímulo qué es un organismo sésil

no habla para nada de localismo en el informe entonces no aparece nada de localismo es un término que han usado ustedes pues no sé para qué

sigue el informe sería de esperar por ejemplo que los mensajes de relaciones públicas en la página web y los medios de comunicación sociales estén en francés e inglés para el público internacional

efectivamente ya se ha modificado eso cuatro meses bueno pero se ha modificado se ha modificado qué quiere

por otra parte no sé si se han leído muy bien el informe porque habla de leeuwarden y todos se han quedado con la boca abierta cuando he empezado a hablar de frisia porque dice

sobre la riqueza y la diversidad de las culturas y las lenguas minoritarias que existen en los países europeos el comité invita a donostia a explorar con más detenimiento

recientemente recomendada para ser capital europea de la cultura en dos mil ocho en el campo de las culturas y las lenguas minoritarias y con los miembros irlandeses

de cultura dos mil trece en el uso de la cultura como un instrumento para superar la violencia y promover la convivencia por tanto como el mismo comité recomienda se nos insta a que nos pongamos en contacto con otra capital europea

todas esas riquezas que aportan las lenguas y culturas existentes en europa si eso es localismo es que también el comité europeo está errado

de decir que la enmienda de adición del grupo socialista

y en la segunda transaccional sí se nos incluyó la enmienda de modificación

a la que yo también envié el texto pero no ha interesado

carmelo barrio jauna usted no confía en la representante que ha designado el gobierno central

porque dicha representante también tendrá algo que decir en el patronato o no ha aprobado ella también el presupuesto del dos mil catorce y

palabras del portavoz nacionalista en el ayuntamiento de donosti de hace escasamente quince minutos

ese órgano consultivo y se le solicitó nombres de personas que tuvieran proyección internacional o sea que usted sabrá con qué fuentes cuenta

las justas mi participación le ha parecido divertida señor maneiro no era esa mi intención

que las capitalidades son oportunidades para conocerse mejor entre los europeos cultura con raíces aceptando lo universal y aportando lo propio porque solo una cultura con raíces puede aportar pero no me negará usted que sabe algo más acerca de frisia y además

intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves ya sean físicos o mentales con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión

o se sospeche que se ha cometido o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras

cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público

o con su consentimiento o aquiescencia hiru konponente beraz sufrimenduak motibazio bat eta funtzionario publikoa

en carne y blanco kepa urra orkatz gallastegiren kasuetan

hoy trece de febrero es el día contra la tortura en euskal herria

con esta iniciativa queríamos traer esas reivindicaciones de reconocimiento reparación y de que se establezcan las garantías necesarias

reivindicaciones principalmente reflejadas en las conclusiones de una visita

realizada en mayo de dos mil once al estado español

el organismo humanitario realizó un informe demoledor

mantendría este informe secuestrado a la opinión pública hasta que

se avino a que se pudieran conocer sus contenidos además de sus importantes recomendaciones principalmente para acabar con la detención incomunicada y para exigir

las denuncias de tortura incluyen algunos hallazgos

con ustedes en el epígrafe referido a detención en régimen de incomunicación

la delegación son palabras del propio informe la delegación recibió alegaciones creíbles y consistentes de malos tratos de diez de las once personas con las que mantuvo entrevistas que habían estado detenidas en régimen de incomunicación en operaciones llevadas a cabo por la guardia civil

en un vehículo desde el lugar de la detención al centro de detención en madrid consistió fundamentalmente en patadas y golpes con porras en la cabeza y en el cuerpo además denunciaron que durante el interrogatorio les colocaron una bolsa de plástico en la cabeza

una práctica conocida como la bolsa y que simultáneamente

físicos prolongados una persona alegó que le amenazaron con abusar sexualmente de ellas de haber quitado sus pantalones y la ropa interior a la vista de la información recopilada parece que el objetivo de los malos tratos alegados era el conseguir que la persona detenida firmara una declaración

antes de que acabará la detención en régimen de incomunicación y confirmar dicha declaración antes de la vista oral arrancar una incriminación o una inculpación a una tercera persona por lo tanto continúa hablando de métodos los oficiales

puñetazos patadas en la cabeza y en el cuerpo estuvo todo el tiempo encapuchada ejercicios físicos en varias ocasiones les colocaron una bolsa de plástico en la cabeza agua por encima de la bolsa habla de una tercera persona con la que también se reunieron y cito

y puñetazos durante su traslado a madrid a cargo de la guardia civil y que en el curso del primer interrogatorio en la calle guzmán el bueno le mantuvieron desnuda

y la golpearon repetidamente también dijo que en el curso de otro interrogatorio

le aplicaron vaselina en la vagina y en el ano y le introdujeron un palo en el recto

abusos sexuales si se negaba a hablar dijo que después de haberla mojado con agua le ataron electrodos al cuerpo y la amenazaron con aplicarle la electricidad el maltrato cesó una vez que decidió prestar declaración

en régimen de incomunicación identificamos a esta persona como bea etxebarria

fue posteriormente inmediatamente archivada sin realizarse absolutamente ninguna diligencia de prueba

el cpt reitera su recomendación de

por parte de oficiales de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado el fiscal adopte las medidas necesarias para garantizar que las denuncias sean investigadas adecuadamente

encarecidamente que lean este informe del comité

al museo de los horrores que relata un órgano internacional

proposición no de ley que hoy presentamos eskerrik asko eskerrik asko arzuaga jauna

arratsalde on guztioi los socialistas vascos tenemos especial interés en que quede clara nuestra posición al respecto del punto que debatimos en este momento y más que entrar en el debate lo que voy a hacer es realizar

de principios éticos que desde nuestro punto de vista debe suponer el suelo por el que debemos comenzar a hablar

un suelo ético que desde nuestro punto de vista debe ser asumido por todos los socialistas vascos hemos denunciado siempre y denunciamos

cuando se han producido debates similares al de hoy han sido meridianamente claros porque denunciamos los asesinatos cometidos por eta

que supone el secuestro denunciamos la limitación de los derechos humanos en cualquier contexto y país denunciamos la tortura que ha sufrido quien ha sido extorsionado por eta y no nos plegamos a un relato tergiversado de lo que ha ocurrido en nuestro país en los últimos treinta y siete años denunciamos cualquier estrategia dirigida a pretender dignificar la actividad terrorista de eta denunciamos con toda rotundidad

y por ello también denunciamos a quienes mantienen la estrategia de denuncias falsas de ellas

a quienes no son capaces de denunciar todas las vulneraciones de derechos humanos denunciamos y queremos que sean juzgados como corresponde quienes se extralimitan en el ejercicio de su función vulnerando los derechos de las personas y con más rotundidad si cabe si estos son funcionarios públicos

a quienes quieren humillar a las víctimas del terrorismo denunciamos a quienes pretenden diluir la responsabilidad real de lo ocurrido en nuestro país en el mal llamado conflicto político

cuando se atacan los derechos fundamentales de las personas sea donde sea y sea quien sea quien lo practique por todo esto

con quienes denuncian siempre y no con quienes eligen el momento y contexto de la denuncia en consecuencia apoyamos que se respete lo establecido en los acuerdos internacionales

que es lo que viene a plantear nuestra enmienda eskerrik asko eskerrik asko unzalu jauna mistoa upyd maneiro jauna zurea da hitza

gracias presidenta nosotros también denunciamos denunciamos el cinismo político

cuando resulta que ese mundo es el que ha avalado la mayor de las torturas que un ciudadano puede sufrir el tiro en la nuca denunciamos por lo tanto el cinismo

al plantear esta iniciativa denunciamos el cinismo político de la izquierda abertzale que pretende presentarse como

cuando resulta que es justo lo contrario es el único grupo que sigue sin condenar la mayor de las torturas el tiro en la nuca

que plantea una iniciativa contra la tortura cuando sigue sin condenar del asesinato la tortura de la extorsión la tortura del secuestro la tortura de privar a alguien de su padre de su madre

o de su hijo esto es lo que nosotros denunciamos y evidentemente vamos a votar a favor de nuestra enmienda de totalidad para que este parlamento ratifique una vez más su posición contraria a la práctica de la tortura y su apoyo a la convención contra la tortura obviamente los demócratas nos oponemos a la práctica

y este parlamento proponemos que muestre nuevamente su plena confianza y apoyo a los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado en particular por su aportación a la lucha contra el terrorismo de eta garantizando así la libertad de todos los ciudadanos

nosotros queremos reconocer su extraordinario trabajo durante tantos años y finalmente proponemos que este parlamento considere y diga que considera

la lacra del terrorismo se adecua al ordenamiento jurídico de un país democráticamente avanzado como es españa y que contribuye de manera decisiva a la erradicación de las organizaciones terroristas cuyo único propósito es anular

por lo tanto defendemos lo que planteamos en nuestra enmienda de totalidad pero sobre todo denunciamos una vez más el cinismo y la miseria moral

torturak ez dituelako behar den bezala ikertu no se trata por tanto solo del informe del comité europeo

ni de las reiteradas opiniones coincidentes de instituciones internacionales

poco sospechosas de cinismo como el relator contra la tortura y el comité de derechos humanos de naciones unidas amnistía internacional o human right watch desde el año dos mil cuatro

que por otra parte les recuerdo forma parte del sistema judicial español ha condenado a españa en seis ocasiones por falta de investigación del estado en denuncias

y el hecho de que el año dos mil nueve españa haya sido condenada cada año

y tenemos muchas pruebas de ello cualquier denuncia de tortura cualquier iniciativa política en este sentido

y sigue siéndolo bajo la acusación de que suponía poco menos que connivencia con eta egia da

akabo salaketa faltsuak la legislación internacional y la interna establecen mandatos claros a los poderes públicos en esta materia

no es una opción es un mandato legal no valen declaraciones genéricas o abstractas la tutela judicial aun siendo necesaria no es suficiente la administración no debe ni puede limitarse a esperar la actuación judicial

debe investigar de oficio las denuncias que se producen eso también es luchar contra las denuncias falsas la grabación audiovisual de la detención

los exámenes médicos por un médico de confianza la comunicación a la familia de la detención y del lugar donde permanece detenido

y además son recomendaciones realizadas por el comité europeo y otros organismos internacionales mejor harían los poderes públicos del estado

por los diferentes comités de ámbito europeo y por los mecanismos de protección de los derechos humanos de las naciones unidas en vez de ponerse en guardia cuestionar la objetividad de los mismos

es uno de los delitos más graves que más repugnancia producen

cometidos por quien tiene conferido por los ciudadanos el monopolio del uso de la fuerza y encomendada la protección y defensa de sus derechos básicos sus víctimas

establecidos por la legalidad internacional para todas las víctimas de los delitos en este sentido la enmienda transada que presentamos los grupos nacionalistas vascos y euskal herria bildu

sí que aun siendo tímidos no son despreciables el informe sobre víctimas de violaciones de derechos humanos producidos

ya establecía un mandato al gobierno mandato que hoy queremos renovar

sobre el impacto de la tortura en euskadi un estudio que permita reparar a las víctimas

para poder avanzar en la superación de una realidad que jamás debimos haber vivido señorías para el día de hoy teníamos un acuerdo más amplio sobre este tema

han abortado en el último momento pero insistimos

tenemos que dar pasos adelante en un camino que necesariamente hemos de recorrer todos juntos pero mientras llegan no vamos a quedarnos quietos acuerdos

durante demasiados años entierre definitivamente la actividad terrorista y permita una convivencia basada en la memoria de lo sucedido la dignidad

lo injusto de la violencia y el valor supremo de la vida y la dignidad humana nada más eskerrik asko iturrate jauna zuzenketarik aurkeztu ez duen

arratsalde on guztioi gracias señora presidenta comenzare con una cuestión formal llama poderosamente la atención señor iturrate señor egibar

sobre el tema en euskadi pero en este parlamento resulta que sus debates han sido extraordinariamente cortos

breves alegando que estos temas se debatían en la ponencia

eran todos relacionados con una condena explícita a eta a su historia a los ataques de kale borroka que en los últimos meses y semanas hemos sufrido en esta comunidad autónoma y llama poderosamente la atención que haya sido el portavoz del partido nacionalista vasco precisamente con este debate

francés español a hablar y a denunciar el ejercicio de práctica de la tortura llama la atención y señor egibar entristece

la realidad si nos abstraemos de otro tipo de mensajes demagógicos es que cualquier persona honrada cualquier persona honrada que defienda el estado democrático y de derecho

está en contra de la tortura y en contra de la práctica de malos tratos cualquier persona que pretenda oponerse con mediana credibilidad al terrorismo o al ejercicio de la violencia

debe exigir moral política y jurídicamente la investigación de cualquier denuncia

de torturas o de malos tratos y como es obvio y conocido a diferencia del grupo proponente nosotros me atrevo a decir que el resto de la cámara condenamos y rechazamos

o mal trato y además pedimos y exigimos que caiga todo el peso de la ley sin contemplaciones

o de malos tratos porque esta es la manera de prestigiar y de defender el estado democrático y de derecho que nos ampara y que hemos defendido a pesar de que algunos han querido a lo largo de estas décadas de democracia subvertir y dicho de una manera

cargárselo lo que no es aceptable

es que aceptemos que se metan conceptos que se metan reflexiones diferentes que merecen análisis diferenciados también en una misma coctelera

el ejercicio de estas prácticas para pretender afirmar para concluir que en españa

sistemáticamente se tortura eso es una rotunda falsedad que merece que merece nuestra más absoluta oposición y en un tema tan serio como este que afecta a personas

a la dignidad del estado democrático y de derecho el cual defendemos aquí y representamos aquí merece al menos un poco de rigor en su defensa al menos un poco de rigor jurídico ya no digo político porque eso sería probablemente pedir demasiado la

de ley antiterrorista y eso no existe en españa no existe una ley antiterrorista esto probablemente es una cuestión menorl pero como es un mantra que se repite habitualmente podría haberl porque en otros países de nuestro entorno

leyes antiterroristas países con una tradición democrática mucho más asentada por el tiempo

y tampoco es cierto que el cpt afirme que en el estado español como se dice en su iniciativa señor arzuaga no tiene intención de

es una rotunda falsedad es una mentira una más porque si vamos al documento del cpt y ahora hablaremos también de cómo se informa

ustedes saben que el cpt organismo que nos merece todo el respeto del mundo

por si alguien lo dudara el cpt se informa a través de muchas consultas se informa a través de consultas a gobiernos se informa a través de consultas a organismos varios y a ongs y a colectivos

denuncia de estas prácticas y uno de esos digo porque hay que hablar también de claro en función de quién informa uno entiende también hacia donde se escora determinados informes behatokia

behatokia es una organización es un observatorio supuestamente

es un observatorio que está conformado por el grupo contra la tortura por etxerat

eta gurasoak y dice para que veamos también estos señores del cpt qué oyen y en boca de quién para que veamos quiénes son estos señores y qué visión cosmovisión de la realidad tienen o del mundo dicen que el pueblo vasco

es el más militarizado de europa tiene el mayor número de presos políticos y la mayor cantidad de exiliados políticos de europa habla de que hay más de trescientos personas asesinadas

fruto de la brutalidad policial o parapolicial de los últimos veintisiete años claro usted es un señor del cpt que viene aquí y le cuentan estas cosas luego va a donde el gobierno de turno y le dice que bueno que no tiene del todo razón pero estamos a la espera

dicen que el conflicto que enfrenta desde hace unos cuantos siglos sic

el rigor con el que hablan el conflicto que enfrenta desde hace unos cuantos siglos en distinta intensidad en nuestro pueblo con los pueblos español y francés

que defienden estos señores y con los que ustedes van hoy de la mano sin necesidad de ir a la ponencia

en boca del señor arzuaga parece que anuncia que en españa hay efectivamente

mentira esa afirmación es mentira se refiere a cosas como menciona la ertzaintza señor iturrate

menciona el cuartel general de la policía vasca de la ertzaintza en arkaute le menciona en varias ocasiones menciona comisarías de la guardia civil y de la policía nacional

mejoradas de que deben tener luz natural de que deben tener las celdas por ejemplo

habla que las celdas de las comisarías de la guardia civil de tres cantos y las rozas en madrid carecen de luz natural habla que las celdas destinadas a la detención ordinaria en el cuartel general de la ertzaintza en arkaute

no estoy minimizando insisto no estoy minimizando el fenómeno de la tortura no se engañen

lo que no vamos a aceptar es la manipulación de documentos y de información sobre una materia muy seria en beneficio de parte

se le olvida que además de este organismo que es muy importante e

que también le merecerá a usted todo el respeto del mundo afirmó en su ultimo informe

o los malos tratos no son sistemáticos en españa

celebra y cito literalmente los esfuerzos desplegados por el gobierno de españa en los planos nacional e internacional para promover los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo fomentar la tolerancia y la solidaridad así como el trato a los detenidos literalmente y al final aquí de qué estamos hablando si desbrozamos toda la verborrea y todo el mensaje a que nos tienen acostumbrados desde la izquierda abertzale que lo único que pretende es manosear la realidad

para vendernos una euskadi que no ha existido ni existirá y así ellos quitarse responsabilidad sobre su gravísimo papel en todo esto que ha sucedido

la táctica de la banda terrorista eta ha sido sistemáticamente denunciar torturas pase lo que pase sean ciertas o no

estos dos lumbreras que pusieron la bomba en la te cuatro

del primero no tenemos constancia me refiero al segundo volumen y que decía se listo

decirle sic al forense que escriba que te han torturado tanto física como psicológicamente cuando estéis ante la audiencia nacional debéis decir que todo lo declarado en dependencias policiales es mentira

el manual del buen terrorista incautado a estos señores

parece que era el jefe militar de aquello de la banda terrorista eta

en una carta también incautada por las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado se refiere

de estos señores y dice que todo lo relacionado con las torturas falsas sufridas por igor en manos del enemigo está en buen camino esta es la realidad de los hechos

y es que en un estado de derecho que nos ampara que nos protege un estado de derecho que es algo absolutamente diferente y está en las antípoda del estado totalitario

que ustedes han defendido políticamente quien la hace también

diez sentencias de amparo del tribunal constitucional solo diez sentencias de amparo desde el año dos mil ocho amparo solicitado

otro por alberto viedma morillas otro por mikel soto nolasco

en buena medida las mentiras que algunos pretenden propagar

es decir cuando el estado de derecho falla porque alguno de sus funcionarios falla además de que merece todo nuestro rechazo y toda nuestra condena merece que caiga sobre él todo el peso de la ley del estado de derecho

inmensa diferencia mire para condenar para rechazar para estar en contra de la tortura de una manera creíble señor arzuaga

no haber defendido nunca no haber justificado nunca

la tortura y eso es lo que usted a diferencia del resto de la cámara no puede decir

con un discurso que va de entre la

de un organismo internacional de un organismo avalado por el consejo de europa hasta la negación e incluso diría la apología de la

están en contra pero puede ser útil están en contra pero una verificación más de la verdadera faz de eso que se llama la marca españa caerá el peso de la ley sobre los testimonios que he leído ahora

caerá el peso de la ley también sobre ellos habrá igualdad ante la ley en la investigación en la persecución

perpetradores de la tortura en los testimonios que acabo de leer

condenados a cuatro meses repito a cuatro meses por un delito de torturas contra josé arregui realizó un alegato muy similar señor sémper es público y notorio que los terroristas mienten se autolesionan denuncian malos tratos estas son las imágenes de la autolesión estas son las imágenes de la mentira esto es una autolesión fingida manual de torturas

hoy el señor unzalu y otros representantes políticos nos dicen

lo condenamos todo denunciamos todo absolutamente el

a adoptar cualquier tipo de responsabilidad propia la mejor manera de no asumir absolutamente en ningún extremo

causado se nos acusa por contra de aplaudir de humillar

similar a lo que hace un organismo como el comité para la prevención

me hablan de credibilidad para hablar sobre cuestiones que vienen a ser de manual mentiras continuas

si aportarían algún documento creíble al respecto el documento que usted aporta

verificado absolutamente por ningún tribunal es de autoría es de paternidad policial en uno de esos informes hablan de sangre en abundancia cómo se consigue sangre en abundancia cómo se hace eso cómo se hace se puede fingir también sangren en abundancia esas son las directrices que presuntamente se

nos hablan tendrían credibilidad para hablar de mentiras de tortura tal vez si establecieran medidas que llevaran luz a esos

si aportarían grabaciones de video o visitas externas de abogados de médicos de familiares de organismos internacionales de observadores externos

al detenido a tener conexión con el mundo exterior aunque sea en la figura del juez

los casos en profundidad y si al menos se pudiera dirimir lo que es de lo que no es tendrían credibilidad para hablar de mentiras una vez llevada a la práctica las recomendaciones de estos grupos internacionales

con la negativa a aplicar centenares de recomendaciones dando la espalda a estos grupos ciertamente considero que carecen ustedes de toda credibilidad las centenas y miles

rehabilitadas y se les debe de garantizar además que lo que sufrieron nunca más se vuelva a producir las recomendaciones que aparecen en este informe son cuestiones de mera humanidad su aplicación conlleva la abolición de un sistema que precisamente

en este país sí sea sistemática porque hay un sistema que es la detención incomunicada que lo habilita usted mencionaba al

y le traigo una cita suya la tortura en españa es más que algo esporádico o

desde la legitimidad que me da haber denunciado en su momento los hechos

los hechos que acabaron con la vida de josé arregui salgo aquí para hacer un homenaje

ingeniero que trabajaba en la central nuclear

secuestrado el día veintinueve de enero de mil novecientos ochenta y uno poco antes de los hechos que usted nos ha descrito durante una semana que estuvo secuestrado el señor ryan manifestaciones multitudinarias en euskadi durante esos días amnistía internacional pidió a eta que liberase al ingeniero ryan durante esos días la esposa e hijos

aparecieron en la televisión pidiendo clemencia a eta eta

mi más sincero homenaje al señor

presidente andrea señor sémper no me haga trampas o por lo menos no las haga a la cámara

primero he utilizado más o menos el mismo tiempo que he utilizado en las intervenciones de los últimos meses desde el mes de diciembre en el que

a la ponencia de paz y convivencia por lo tanto no he dedicado más y puede usted repasar

es más no ha llegado a ponerse en amarillo el reloj segundo la proposición no de ley que traemos hoy a cuento y lo he dicho en mi primera intervención primero es de eh bildu no la hemos traído nosotros está presentada en el mes de mayo

en el mes de mayo entonces ni el partido socialista había abandonado todavía la ponencia por lo tanto no estábamos en esa dinámica para nada

a cualquiera de las últimas presentadas a ese respecto y sí no es verdad que

el segundo punto de la enmienda habla de remitir a la ponencia por lo tanto no difiere mucho de la que pudo presentar el señor egibar la última vez o yo

por otra parte usted sabe que yo he empleado

en denunciar a eta y muchos minutos en dirigirme

exigiendo el reconocimiento del daño y el ejercicio del principio de responsabilidad por lo tanto no intente confundir ni a nosotros ni a la opinión pública

elementos de uno y otro lado para denunciar torturas sistemáticas no nosotros por lo menos yo he dicho bien claro

del cpt no habla de torturas sistemáticas pero ya que usted ha citado

yo le voy a citar las seis sentencias del tribunal de derechos humanos de estrasburgo que repito es parte del sistema judicial español

asunto martínez sala y otros contra españa de dos de noviembre de dos mil cuatro

de ocho de enero de dos mil nueve sentencia del tribunal de derechos humanos asunto san argimiro de veintiocho de diciembre del dos mil diez

sentencia del tribunal europeo de derechos humanos de veinticuatro de julio de dos mil doce y sentencia del tribunal europeo de derechos humanos

al reino de españa por no investigar suficientemente los casos de tortura yo creo que eso es algo que primero

debe preocupar a cualquier demócrata y lo que es más importante debe ocupar a cualquier demócrata señor sémper y debe ocuparnos a todos a usted también y yo me alegro de escucharle que le preocupa y que lo denuncia pero debe no solo preocuparnos debe ocuparnos los poderes públicos tenemos que actuar se nos exige actuar por otra parte

nos acuse a algunos o al resto de frivolizar sí usted habla de frivolizar de falta de rigor en las explicaciones cada uno es libre usted no tiene que escribir pero usted dice y luego no recuerda lo que ha dicho

usted nos ha acusado a todos de frivolizar y nos ha acusado y acto seguido sin solución de continuidad hablando del informe se refería a la falta de luz en los calabozos de la academia de arkaute

en los calabozos de la guardia civil ni de la policía nacional simplemente con que se pongan las medidas que exige el informe del cpt es suficiente fin de la incomunicación

yo para terminar solo les pido respeto para las víctimas para todas las víctimas esas declaraciones que hacemos todos de humanos universales para todas las personas y en todas las situaciones mire los torturados

también tienen derecho a la verdad la justicia y la reparación como las víctimas del terrorismo de antes de mil novecientos setenta y ocho y las de después

merecedores de los mismos principios y de la misma atención aquí señorías no nos rasguemos las vestiduras se ha torturado a terroristas y a inocentes

eran metidas un día en la comisaría de indautxu en su día

paralíticos personas absolutamente inocentes y esas personas

a pedir en la proposición no de ley y no pedimos otra cosa y ya que estamos recordando a víctimas

muy relacionado con las denuncias de tortura yo quiero recordar también las palabras de josé maría lidón

nos decía una frase la policía española no trabaja a través de la investigación la policía española trabaja de oído sacude al detenido y pone la oreja

josé maría lidón no pudo seguir diciendo y defendiendo

señor iturrate yo lo siento mucho por usted pero no es el

ya siento que se dé usted por aludido cuando digo cosas que le puede sonar a que son relacionadas a ustedes sobre todo cuando insisten en firmar cosas de este tipo con los señores de eh bildu

que al menos requiere una explicación hasta ahora despachaban todos estos temas insisto todos no

o amenazas y coacciones y ataques de kale borroka contra sedes del partido popular lo despachaban diciendo

por primera vez lo hacen de la mano de bildu una enmienda de transacción enhorabuena señores de bildu van ustedes arrastrando

lo hacen ya afirmando cosas y pidiendo cosas añadidas

allá usted por qué lo ha hecho y allá usted por cuáles son los motivos que le llevan a ello miren y termino ya

ni ponencia de paz y convivencia ni hablar hasta el amanecer

aquí no hay manera de entenderse seamos claros no hay manera de entenderse

en dos planos completamente diferentes y que no se tocan

se lo voy a volver a repetir nosotros condenamos rechazamos repudiamos cualquier práctica

sea el detenido miembro de eta miembro del gal miembro de cualquier organización terrorista o criminal lo rechazamos lo condenamos y lo repudiamos

y más alto se lo podría decir pero no me pida ese esfuerzo no la diferencia es que usted usted no tiene legitimidad política para rechazar para condenar una práctica violenta ninguna y mucho menos tampoco

y no la tiene porque usted a diferencia del resto de esta cámara justifica ampara la práctica de la violencia terrorista en manos de eta

que para jugar en igualdad de condiciones que los miembros de esta cámara

que ninguno de los asesinatos cometidos por eta tienen legitimidad ninguna ni validez

no podrá venir aquí políticamente a condenar ni a rechazar

porque no está en el mismo plano de legitimidad democrática que nosotros señor arzuaga porque no lo está

y que merecen su retórica más alambicada para no tener que condenar y hay otras violencias hay otro tipo de violencia que requiere toda su contundencia

no tiene un pase por eso le digo que para venir a esta cámara

primero tiene que hacer un recorrido que lamentablemente

no tienen ninguna gana de recorrer y eso es una pena para esta tierra seguro pero sobre todo

langabezia handitzen ari da beti ere sería una irresponsabilidad permitir que una empresa histórica como la naval de sestao

con una capacidad profesional altamente reconocida a nivel europeo y mundial y la más importante en cuanto al volumen en la creación de empleo en la margen izquierda siguiera sin contratar la construcción de ningún barco

entrará en una situación muy grave que puede poner en cuestión el futuro del astillero el último bastión industrial que da empleo a más de mil quinientos personas entre empleo fijo y eventual

y a toda la margen izquierda comarca ya duramente castigada con el paro hori dela eta eusko legebiltzarrak beharrezkotzat jotzen du